por tanto estamos ante viviendas protegidas en alquiler que son privadas viviendas que no son propiedad ni del gobierno ni de alokabide

es una relación jurídica privada viviendas con una calificación de protección oficial de treinta años

tenía la obligación de destinarlas a alquiler durante los doce primeros años a partir de ese momento

o su venta y mientras tenga la recalificación los compradores deberían de cumplir

que así se requieran y los arrendatarios gozarían del derecho preferente de adquisición del artículo veinticinco de la ley de arrendamientos urbanos

de transmisión de viviendas de protección oficial el gobierno tendría la prioridad dentro de esa adquisición y

por lo tanto en este momento jurídicamente se circunscribe y se limita al visado de los nuevos contratos y a verificar

en los nuevos contratos cumplen las condiciones que requiere la normativa de vivienda de protección oficial por lo tanto estas son las reglas de juego este es el campo de juego y hau guztia horrela izanda benetako

y por otra parte ante las enmiendas que se habían presentado las tres enmiendas o la tres en uno que se ha presentado como transaccional claro es que nadie está diciendo que el gobierno

nada lo que se está diciendo es que actúe en base

a las reglas de juego y a la normativa que tiene yo le agradezco que a cambio de nuestro voto nuestra abstención usted introdujese

cumplimiento de la normativa de vpo pero si es tan obvio no sé por qué ustedes no la han introducido o si es posible que esa normativa esté en contradicción con algunos puntos que ustedes en párrafos preferentes

gracias de nuevo señora presidenta hombre es que que hay que cumplir la ley si quiere lo ponemos en todas las iniciativas a partir de ahora pero

es tan obvio que creo que no hace falta ponerlo lo que pasa que usted no lo pone

usted lo pone esa enmienda es porque lo que defiende es que es lo único que puede hacer el gobierno vasco

y eso es con lo que yo no estoy de acuerdo se le puede pedir que cumpla la ley

pero también otras cosas es verdad que es un tema concreto y determinado y unos vecinos concretos y determinados

a la vez que se hablan de temas generales se intentan buscar soluciones a problemas concretos y determinados en la medida que sea posible y siempre dentro de la legalidad evidentemente es verdad que mucho de los temas que aquí han surgido están siendo tratados en la ponencia de vivienda como el tema del alquiler que es verdad que para algunos

el único sistema a la hora de garantizar una vivienda con fondos públicos y desde este grupo lo hemos dicho y lo vuelvo a reiterar tiene que ser

no el único aunque sea el prioritario y la enmienda que ha presentado bildu tendría sentido

que es si decide vender la ute el gobierno vasco las va a comprar

y ahí podría tener sentido esa enmienda lo que ocurre es que yo lo he dicho

se decía un alquiler para vivir tranquilo en benta berri podrá acceder a una vivienda de calidad con un alquiler accesible

conservación de la vivienda y además se le reconocerá en su contrato que trascurrido dicho periodo es decir los doce años tendrá el derecho de adquisición preferente a su vivienda de acuerdo con la legislación

qué ocurre que cuando se le presenta el contrato el gobierno vasco ha desaparecido el contrato a firmar y no aparece ya en ese contrato esa opción de compra

y que cuando se le pidieron explicaciones a la ute la ute lo que dijese

pasa al siguiente y ellos muchos firmaron con la intención de reclamar

y de hecho antes de que haya transcurrido un año desde que entran ya forman la asociación fíjense

y el gobierno vasco que sí había estado presente al principio después desaparece y es verdad que ha ido habiendo reuniones pero también es verdad que no se les han dado las soluciones porque claro

en este momento cuando llegue el dos mil quince que tienen que estar esperando siempre a cuál va a ser la intención de la empresa y eso es en lo que nosotros creemos que sí que puede mediar el gobierno vasco

yo en esta institución y en otras instituciones en las que he estado

una cosa es exigir imponer que no se puede porque legalmente no se tiene esa posibilidad y otra cosa es mediar y también he visto modificaciones legales para solucionar problemas concretos y determinados por ejemplo

para solucionar problemas determinados a unos determinados prejubilados porque tenían un problema muy determinado

la igualdad de condiciones y yendo a la generalidad porque además yo creo que en el tema de las permutas dar la posibilidad que eso se plantee

a la propia ute o que se plantee también con las viviendas eso es algo que está saliendo también en la ponencia de vivienda

y porque tiene que existir esa posibilidad de poder cambiar y si en este caso determinado se puede mantener hay esa posibilidad de permuta y se puede mantener en el mismo entorno

que si hay voluntad de intervenir más allá del cumplimiento de la ley el gobierno vasco puede hacerlo no puede imponer evidentemente porque

relación privada pero todos sabemos que cuando las instituciones intervienen y median tienen más fuerza
que cualquier otra cosa o que cualquier otro particular nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea beitialarrangoitia andrea zurea da hitza

que las cosas no se hicieron bien es una evidencia es decir

de que estén concluidas las viviendas a la firma del contrato ya hubo realmente

una suerte de engaño dejémoslo así y de entonces hasta aquí es verdad que los planteamientos del colectivo han ido

atemperándose porque si bien había un momento en el que lo de la opción de compra se esgrimía como el elemento esencial de la reivindicación puesto que habían sido

por lo menos conducidos al error en ese punto ahora parece ser y lo ha dicho la señora llanos

sea en alquiler que es coincidente con los postulados de prácticamente el arco parlamentario en materia de vivienda que sea en alquiler

en los términos en los que está por eso decíamos bueno y no se puede plantear la extensión de la calificación más allá del tiempo previsto para que tenga ese carácter

que tenemos bastantes coincidencias en materia de política de vivienda aquí lo que ocurre es que

de un caso concreto hacemos un análisis del caso concreto porque efectivamente tiene un pecado original un vicio de origen

el daño causado y otra cosa es que a partir de un caso podemos obtener la experiencia necesaria para poder formarnos opinión sobre las cuestiones generales porque efectivamente legislar hay que legislar para todos igualdad de trato principio

irrenunciable y por lo tanto no se trata de buscar una fórmula acomodada a una colectivo concreto que tenga una situación de excepción se trata de que a partir de una situación que viene viciada que por lo tanto no se puede volver al momento original se trata de ver de qué manera se puede compensar ese daño cómo

alguna garantía sea en alquiler esa es la vocación de la empresa perfecto si la empresa tiene esa vocación pero que no se deje al albur de las anualidades si la gente está cumpliendo

que facultan para el acceso a la vpo que en un momento dado cuando pierdan esa calificación se puedan encontrar

y que los saquen del lugar dado que esa promoción

que lo mantuviera en el tiempo que su vocación fuera conservarlo en el tiempo de que accedan a ella las personas que reúnen socioeconómicos para entrar en ese rango y el día de mañana efectivamente

en el año veintiocho cuando los

parece ser que han enajenado mucho patrimonio pero ese no lo enajenan se ve que es una gallina que da buenos huevos

no creo que veamos cumplir ese acuerdo tiene reversión porque es derecho de superficie en definitiva a qué hemos venido aquí a buscar un tratamiento personalizado y singular para un colectivo concreto porque en fin porque son especiales no sino a tratar de buscar una solución a un problema

momento en la génesis pues en fin ha creado este tipo de cosas una solución que por supuesto no puede tratar de sortear los ámbitos legales que rodean al asunto pero como he dicho antes ha habido conversaciones por cierto yo también tengo noticias de que el gobierno con los vecinos no estaba reunido pero bueno no pasa nada no pasa nada si es que efectivamente

lo que nos mueve es el hecho de que hay un número importante de personas afectadas por un asunto no de ahora sino de tiempo atrás

y nosotros nos hacemos eco ya sé que los demás también son sensibles a ello pero bajo las diferentes posturas se trata de ver hasta dónde podía alcanzarse

entiendo por los gestos del consejero que sí lo va a hacer quiero decirle señor urkola por último

donostia dijo lo siguiente primero estimar la concurrencia de un interés público local en la defensa de los intereses actuales de los arrendatarios y arrendatarias de las viviendas de protección oficial del barrio de benta berri de donostia san sebastián centrados en la permanencia de las viviendas que ahora ocupa

de compra como este es un asunto que ha decaído por el trascurso del tiempo no lo menciono pero sí

reconocían el carácter de interés general de cara a encontrar
una garantía de permanencia en el lugar y eso es a lo que hemos venido nada más y muchas gracias eskerrik asko itsaso jauna

únicamente para poner voz al señor consejero aunque luego en ninguna otra comisión se le

tiene voz o no voto o no sé qué historias como la última pero bueno el señor consejero ya ha indicado y se lo aclaro que el gobierno nunca ha dicho que todavía se haya reunido

con los vecinos lo que el gobierno ha dicho es que sí se le ha trasmitido la voluntad de la ute benta berri de seguir en alquiler

y a partir de ahí seguirá gestionando seguirá gestionando y usted señora nerea llanos comentaba

a partir de cumplir la ley puede hacer otras cosas nosotros lo que le décimos es que haga las cosas cumpliendo la ley porque

un planteamiento sencillo ante los vecinos de decir sí sí el gobierno les tiene que dar una solución y cuando se acercan

entonces es una situación bastante ventajista yo no sé si fueron engañados o no fueron engañados no sé si fueron no estuve allí y no voy a entrar en ese debate porque desconozco del mismo modo que tampoco voy a criticar señor itxaso el hecho de que en aquel momento

tomaron todas estas decisiones y es muy sencillo opinar fuera de los contextos entrando a la enmienda

aplikatu dezala babes ofizialeko etxeena en su enmienda lo que ustedes dicen es que intervenga que intermedie nosotros le décimos que gestione sí sí que gestione pero

que no le corresponde y para buscar

yo no habré respondido creo que ya he respondido y bastante al tema de la compra de las

de vpo pero lo que no he oído en esta hora que llevamos es una solución concreta que planteen ustedes no he oído

a los vecinos pero a nosotros no nos han hecho llegar ninguna yo tampoco la tengo lo único que le digo al gobierno es que trate de buscarla bien pero desde el reconocimiento

y los que no estamos capacitados trataremos de llevarlo adelante la relación entre las permutas

pero no se le puede negar que lo tengan que hacer dentro de la normativa de vpo

es posible que lo hagan entre ellos es una relación jurídico privada ningún problema

en el escrito dicen que tengan derecho a inscribir en el registro es que ya lo tienen

y ha hecho una interpretación que señor itxaso yo no hacía esa interpretación pero si es así usted sabrá por qué es

firmada por el señor arriola en el que se le reconocen seis meses usted hace la interpretación de que un contrato se acaba cuando se le notifica no sé si esa la interpretación usted sabrá mejor porque fueron ustedes quienes lo hicieron y los que ahora piden

modifique situaciones similares claro tengo que reconocer que ha habido una mejora por lo menos cumpliendo la normativa

direnean por cierto aquí está el escrito en el que dice que interés público local pero bueno el propio gobierno en respuesta

semper después de decir el cumplimiento dice tiene voluntad política de buscar soluciones de todo tipo en defensa del interés general y con sujeción estricta legal de aplicación si están de acuerdo dígaselo a los vecinos dígaselo no obvie el cuarto punto del cumplimiento de la normativa y les tengo que reconocer

que votaría a gusto a favor de esta enmienda votaría a gusto a favor porque sería una enmienda a la totalidad a la gestión que se ha realizado sobre este asunto y como en alguna

de este grupo político pero la responsabilidad

porque estaríamos engañando a los vecinos besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko

presidenta señorías que en el país vasco se haya puesto en marcha una política fiscal de país

llevamos treinta y cuatro años de autogobierno y si no se ha hecho antes no ha sido por falta de competencias desde mil novecientos ochenta y nueve

de competencias en armonización colaboración y coordinación fiscal la realidad demuestra que si no se han utilizado no ha sido por falta de oportunidades y por falta de necesidades los problemas surgidos con los incentivos fiscales

así lo ponen de manifiesto han hecho falta veinticuatro años y una tenaz voluntad del partido socialista para que el veintiséis de septiembres de dos mil trece esto

aquel pleno de fiscalidad producido en una coyuntura de debilidad y soledad del actual gobierno vasco se hizo a regañadientes con muchas cautelas con más limitaciones de las que eran necesarias algunos llegaron a ese pleno forzados por la existencia de otros acuerdos y otras necesidades y con unos antecedentes fiscal foral que amenazaban con perpetuar inercias se aprobaron treinta y dos resoluciones sobre aspectos muy diversos de fiscalidad

las apelaciones a la importancia de la materia concreta de la lucha contra el fraude fiscal no han cesado la puesta en marcha de las resoluciones aprobadas

la misma suerte hace unas pocas semanas a petición del grupo parlamentario socialista en esta cámara comparecía la comisión de lucha contra el fraude fiscal

una comisión compuesta por representantes de la tres diputaciones forales y del gobierno vasco

la lucha contra el fraude fiscal y una comisión que a nuestro juicio evidenció la necesidad del impulso político

y para disponer de medios y herramientas necesarias una de esas necesidades de impulso político los socialistas la hemos situado en cómo hacer efectiva una parte de la resolución seis cuando plantea anual de lucha contra el fraude que establecerá unos objetivos evaluables en actuaciones y resultados y que estos objetivos evaluables en actuaciones

deberán ser informados a las tres juntas generales y a este parlamento vasco como sus señorías pueden apreciar en el plan que se aprobó a finales de marzo por la comisión en él no se precisa un número concreto de actuaciones en los capítulos de obtención de información tributaria

de regularización y de cobro y tampoco se fijan unos resultados en términos de recaudación en aquel pleno de fiscalidad de dos mil trece se dieron diferentes consensos sobre las diferentes resoluciones pero si alguna rebosó apoyos fue la de la lucha contra el fraude fiscal

la comisión de lucha contra el fraude fiscal necesita rodaje que hay que tejer complicidades de trabajo y que hay que homogeneizar datos

en el año dos mil quince cuando se fijen esos objetivos evaluables en actuaciones y resultados y hemos traído aquí esta iniciativa porque

la responsabilidad política de la lucha contra el fraude está en la política necesita el impulso de la política y esta facultad y responsabilidad está depositada

es de nueva creación la lucha contra el fraude no en las diputaciones en sus haciendas en sus servicios de inspección fiscal hay datos

hay resultados hay herramientas para situar objetivos y esto debe hacerse ya la agencia tributaria de españa

como referencia ya que el dos mil catorce todavía no ha finalizado publicó el doce de marzo del año dos mil trece en el boletín oficial del estado cuáles eran sus objetivos y los cuantificó

lo que suponía por un lado un once coma siete por ciento más que lo obtenido en dos mil doce y lo que finalizó ese objetivo con

por lo que se ha puesto de manifiesto algo que ya viene sucediendo desde legislaturas anteriores y con gobiernos diferentes en una secuencia importante de años que se pueden fijar objetivos de recaudación y que estos incluso pueden ser cumplidos y en este caso hasta mejorados en ese mismo boletín oficial del estado al que hago referencia también se publicaron cuáles iba a ser las principales

de dicha agencia tributaria no creo que nuestro sistema de inspección fiscal sea de menos nivel que el de españa y no creo que en el país vasco tengamos menos determinación para luchar contra el fraude fiscal y para ofrecer objetivos y resultados que forman parte

como sucede en españa a esta proposición no de ley se ha presentado una sola enmienda por el grupo nacionalistas vascos

y proponemos los socialistas no quiere concretar nada no quiere que la comisión esté arropada e impulsada por la determinación política

que este objetivo se someta a la evaluación y a la responsabilidad política que pudiera derivarse de sus resultados si se llegara a votar la rechazaremos aunque espero que a esa situación no se llegue porque antes se haya apreciado

proposición no de ley que estamos presentando señorías estamos avanzando en la lucha contra el fraude fiscal estamos avanzando política y socialmente pero también hay que hacerlo económicamente a la política le corresponde demostrar con hechos

y esto cuando se habla de recursos públicos es nuestra obligación cuantificarlo esto es lo que proponemos y lo que décimos que hay que hacer en el año dos mil quince señorías la lucha contra el fraude fiscal tiene cuatro pilares uno

la sensación de control de que se sabe lo que se está haciendo

de que nuestros servicios de hacienda nuestros servicios de inspección ejercer el control correcto adecuado público transparente abierto y eficaz de lo que son los contribuyentes en

de la lucha contra el fraude es la localización del defraudador efectivamente hay que localizar

y para eso hay que situar herramientas y hay que situar objetivos en tercer lugar es la penalización del fraude ciertamente si

tiene que haber también una herramienta de penalización del fraude y la cuarta es la recaudación por fraude y esta es la que hoy sometemos a su consideración

si hay una localización del defraudador y si hay una penalización del fraude tiene que haber unos resultados económicos cuantificables tiene que haber una recaudación

no de los técnicos sino de la política los técnicos tienen que estar al servicio de la política los técnicos tienen que hacer su función técnica tienen que hacer su trabajo de campo

la que tiene que situar los objetivos la que tiene que exigir responsabilidades y la que tiene que dar herramientas para que todo esto se pueda llevar

es responsabilidad de todos y todas los que aquí

esto es lo que estamos planteando con esta proposición no de ley esto es lo que estamos proponiendo que este parlamento se implique más dé una vuelta de tuerca a la lucha

que deje de hacer solo declaraciones y testimonios sobre la importancia de la lucha contra el fraude fiscal sobre la solidaridad social

fiscal de toda la ciudadanía y que pase a escenarios mucho más ejecutivos

y mucho más visibles es obligación de la política es obligación de este parlamento objetivos de recaudación de fiscalidad y poder conseguirlos en esa lucha contra el fraude fiscal este es el planteamiento esta es la propuesta

y que esperamos sea apoyada por el conjunto de los grupos de esta cámara muchas gracias eskerrik asko prieto jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eusko abertzaleak

tenemos que ser conscientes de que es la primera vez que hacemos un plan conjunto entre las tres administraciones

de ese plan conjunto y que estamos adaptando nuestros sistemas informáticos homogeneizar la información que vamos a dar es complicado nos decían señor prieto que el primer año en algo tan complejo como este plan podamos tener objetivo sobre la base de que no tenemos datos de años anteriores

tenemos que esperar a tener datos evaluados de años anteriores

unas estimaciones para futuros planes con un mínimo de rigor eta hori da gure legez besteko proposamenean esaten duguna

esan euskuen el primer año es complejo poder hacer

behin proposamenak egiten no podemos estar señor prieto continuamente

de qué es lo que tiene que hacer cuando hace catorce meses en esta cámara por impulso político señor prieto

apoyo de las distintas formaciones y de los distintos grupos parlamentarios

que tenía que ser una comisión técnica de carácter exclusivamente técnico quien tenía que constituir y trabajar en esta lucha contra el fraude fiscal el impulso político y la voluntad política quedó claramente manifestada hace catorce meses en un pleno monográfico que se desarrolló en esta cámara ahora nosotros decidimos que sean los técnicos quienes tienen que trabajar

dejémosles trabajar y además si les invitamos a esta casa para
sus opiniones sus criterios tengamos en cuenta también qué es lo que ellos consideran que se debe hacer eskerrik asko eskerrik asko

creo que se han dicho algunas cosas que merecen ser rebatidas sobre todo en lo que se refiere a la primera intervención del señor

ha puesto en valor la política fiscal de país que supuestamente disfrutamos

que la política fiscal que tenemos los vascos no es ni la mejor posible ni es de país y usted efectivamente ha puesto en valor aquel pleno inolvidable del mes de septiembre del año pasado

upyd votó a favor de algunas de las propuestas de resolución planteadas conjuntamente por el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

interesantes que iban en la buena dirección y por lo tanto y por ello votamos a favor de ellas efectivamente en lo que se refiere a la mejora de la fiscalidad más progresiva y más progresista y también en relación

en marcha un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal

upyd ya en dos mil nueve propuso en este parlamento la puesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y lo cierto es que

fue rechazada por una mayoría de grupos pero en todo caso esas propuestas de resolución o algunas de las propuestas de resolución

un avance y por eso no tuvimos ningún problema en apoyarlas de hecho solo upyd votó a favor de esas enmiendas esas propuestas de resolución firmadas conjuntamente entre el grupo socialista

respecto a la fiscalidad que tenemos a día de hoy ya digo que esta fiscalidad es claramente mejorable no es todo lo progresiva

que debería ser es decir el pacto que alcanzaron el partido socialista y el partido nacionalista vasco no fue un pacto lo suficientemente ambicioso a través de esa reforma fiscal pactada entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi lo cierto es que no se iguala a la imposición a las renta de capital con respecto a las rentas del trabajo

no está armonizado con el resto del estado y el impuesto de patrimonio sigue sin estar armonizado a día de hoy lo cierto es que este asunto en concreto lo debatimos

para hacer todo lo posible y armonizar ese impuesto que queda a día de hoy pendiente de armonizar lo cierto es que esa reforma fiscal no propuso y no planteó la armonización del impuesto de patrimonio y desde luego señor txarli prieto si algo es evidente es que este parlamento decide la fiscalidad de los vascos por mucho que ustedes quieren hacer propaganda en relación a esta cuestión y quieran vendernos esta idea lo cierto es que a día de hoy

de los vascos se decide en las juntas generales

esto es así nosotros seríamos partidarios de que sea este parlamento quien decida la fiscalidad pero lo cierto es que

este hecho no se ha producido en absoluto más allá de que haya determinados pactos políticos momentáneos o temporales que puedan asegurar

en euskadi lo cierto es que mientras las competencias fiscales residan en las juntas generales de los territorios históricos la desarmonización será un hecho o una amenaza porque esos pactos fiscales esos pactos políticos

la desarmonización a día de hoy es una amenaza y seguirá siendo una amenaza mientras las competencias en fiscalidad se encuentren en manos de las juntas de los territorios históricos por lo tanto nosotros volvemos a reivindicar aquí las competencias fiscales puedan residir finalmente en este parlamento y que sea este parlamento quien decida la fiscalidad de los ciudadanos vascos para defender una sola política fiscal en euskadi que garantice la máxima igualdad de los ciudadanos en relación a la lucha contra el fraude fiscal de acuerdo obviamente con el señor prieto en que debe hacerse más porque puede hacerse más y de acuerdo también con la necesidad de que en fin se ponga en marcha cuanto antes o funcione

manera posible ese plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal efectivamente parece ser que ya está en marcha pero lo cierto también es que está trabajando a ritmo

tener datos ciertos en relación a qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se pretende hacer de cara al futuro y por supuesto de acuerdo también en mejorar la interconexión de datos tributarios entre las diputaciones forales y en relación a la iniciativa planteada por el señor txarli prieto estamos de acuerdo estamos de acuerdo

y a las diputaciones forales a que la comisión de lucha contra el fraude incluya en el plan para el ejercicio dos mil quince una previsión de recaudación que pueda ser evaluada

o no dijera eso la propuesta de resolución que ustedes firmaron y aprobaron me parece que es un objetivo que merece la pena ser apoyado y por lo tanto vamos a votar de manera favorable esta iniciativa del grupo socialista en la justificación de esta iniciativa se dice que sería muy importante que en los presupuesto del gobierno vasco y de las tres diputaciones se incluyera en el capítulo de ingresos

por lucha contra el fraude en el ejercicio estoy también totalmente de acuerdo yo mismo en la comparecencia del consejero de y finanzas del gobierno vasco le pregunté por esta cuestión le pregunté si había datos en relación a esta cuestión si de alguna manera podíamos saber cuáles eran los ingresos planteados en este proyecto de presupuestos que vendrían de la lucha contra el fraude le pregunté sobre la cuestión y lo cierto es que el consejero

absolutamente nada pero el propósito me parece ambicioso y por eso votaremos a favor de la iniciativa planteada el grupo socialista ojalá pueda servir para hacer más y mejor en relación a la lucha contra el fraude fiscal todo lo que hagamos es poco
y por lo tanto de acuerdo con la iniciativa gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraen ordezkaria danborenea jauna zurea da hitza

pero bueno supongo que cuando se presenta algo con el titulo de lucha contra el fraude fiscal

todos hacemos lo que él ha planteado hace tiempo tarde mal

ya lo siento señor maneiro ahora tenga cuidado porque se está volviendo usted algo nacionalista porque esto de que

el parlamento vasco sea el que regule la igualdad de los vascos a lo mejor en su partido

le dicen algo digo por comentar tampoco voy a entrar aquí en la dinámica en la que nos están intentando meter algunos

que en este caso por lo menos en base a los datos de los técnicos porque es que

es el que pone la cantidad más alta que supuestamente quiere recaudar y evidentemente no es eso

pero es evidente que eso será en base a lo que hemos decidido entre todos

que manejar las cosas y desde luego cuanto menos injerencias haya de políticos

somos los que lo venimos planteando en este parlamento desde hace mucho tiempo y yo tengo que decirles que me he leído hasta cinco veces la propuesta y la enmienda y digo cinco porque después del arduo debate que he

sigo siendo incapaz de ver exactamente cuál es la diferencia y he llegado a la conclusión

el partido socialista lo que quiere es una cantidad global en el plan

por cada una de las áreas de actuación en la aplicación del plan

que evidentemente la suma de cada una de ellas da el global

no podía ser tan complicado llegar a un acuerdo entre ambos

que recoja los resultados previstos con las previsiones para cada una de las áreas y que luego además aparezca la suma final de todas ellas con lo cual ya en el plan tendríamos

yo creo que todos estaríamos encantados de tener esa información sería bueno para todos y por lo tanto qué quieren que les diga nosotros estamos a favor de las dos cosas nos parece quizás tenga mejor relación

señora gorospe no se ponga nerviosa el sistema

sistema es el mismo otra cosa es que la gestión sea mejor o peor no en el país vasco

o no que pueda ser mejor o peor y otra cosa es que los datos que pueden ser mejor comparativamente en el resto de españa pueden ser debidos a una mejor gestión o no o a lo mejor aquí hay más fraude fiscal que allí

digamos recaudar proporcionalmente más por lo tanto no nos pongamos nerviosos

fiscal que tenemos es el mismo las diferencias son en algunos impuestos eskerrik asko damborenea jauna

eskari bat egiteko bere hitzetan tal y como se establece en la resolución parlamentaria número seis del famoso

veintiséis de septiembre del dos mil trece honek

jarri behar ditugula teknikarien esku gizartearen esku sistema bera hobetzeko miren en la lucha contra el fraude fiscal

algunas con resultados a corto plazo como son las dirigidas a la obtención de información y las actuaciones de regularización y cobro y otras a más largo plazo principalmente las preventivas pero parece que las de corto plazo son las que gustan quizás sean estas las más llamativas es verdad y con las que algunos

pero sin duda no son las que más contribuyen a hacer un sistema fiscal mejor y más justo la lucha contra el fraude es mucho más que ver en qué y qué se recauda del fraude cada año

es cierto se habla de objetivos evaluables en actuaciones y resultados pero los miembros del consejo y la propia diputada de hacienda de gipuzkoa que una vez más fue la única diputada de hacienda en comparecer en este parlamento ya dijeron que estaban en fase de homologar los datos de las tres haciendas forales

esfuerzos y resultados es decir que están trabajando en poder tener datos homologables

mal que les pese comparar los datos de fraude descubiertos resulta harto complicado porque las administraciones no tienen los mismos criterios para medirlos

denuncian que cada año la agencia tributaria fija un objetivo en la lucha contra el fraude un doce por ciento por debajo de los resultados de los años anteriores

al gobierno presumir de un aumento espectacular de los resultados

es decir en los años de la crisis gestha que son estos técnicos del ministerio de hacienda de la agencia tributaria destaca además que los esfuerzos de la agencia por maquillar los resultados también se consiguieron modificando aleatoriamente cada año los criterios de imputación de los ingresos

el tribunal de cuentas del reino de españa hau ez da gure eredua izango inola ere ez

en primer lugar me dirijo al señor maneiro para agradecerle su apoyo a la iniciativa que hemos presentado en segundo lugar

que la diferencia fundamental entre nuestra iniciativa y la enmienda del partido nacionalista vasco es que nosotros queremos fijar un objetivo en el año dos mil quince

un objetivo en el dos mil quince dice se verá se hará si es posible cuando se estime esta es la diferencia básica tener un objetivo en el dos mil quince o no tenerlo en tercer lugar a la señora

le diré que y también explicaré más cosas a continuación no he valorado la acción de la agencia tributaria en relación al objetivo económico de la lucha contra el fraude no he valorado

de que se puede hacer no como otra cosa con independencia de cuál sea el resultado con independencia de cómo se llegue a ese resultado

he puesto como ejemplo que se puede y se debe hacer y lo que parece claro es que usted no quiere que se haga no quiere que se fije ese objetivo

que nadie se parapete ni detrás de la comisión de lucha contra el fraude fiscal

en disertaciones tangenciales sobre el fondo de lo que se está planteando en este país existen instituciones que tienen capacidad de unos objetivos económicos de lucha contra el fraude fiscal y de dar después explicaciones sobre hasta dónde han llegado y esto se hace luego esto se puede hacer también en el país vasco fíjense no si se puede hacer si se debe hacer en el país vasco miren fue el partido socialista el que pidió

de la comisión de lucha contra el fraude fiscal una comparecencia que se hizo en la comisión de hacienda el día veinte de octubre de este año en esa comparecencia que hubo muchas intervenciones y que además hubo varias intervenciones por parte

de la comisión de lucha contra el fraude los miembros de la comisión de lucha contra el fraude esos técnicos que están establecidos por las tres diputaciones y por el gobierno vasco si tanto les queremos respetar y si tanto les queremos escuchar

dijeron entre otras cosas las siguientes cuando yo les interpelé a si tenían que fijar un objetivo económico de lucha contra el fraude fiscal dijeron son otros los que tienen que decir si se puede cuantificar presupuestariamente los objetivos de recaudación porque efectivamente ellos como técnicos no querían ni podían ni debían asumir la responsabilidad política

en la cuantificación de la lucha contra el fraude fiscal efectivamente esta es una

de la política la comisión de lucha contra el fraude tiene la facultad técnica de establecer su programa de trabajo y las acciones oportunas y pedir las herramientas

ellos son los competentes para hacerlo pero ellos no son los competentes políticamente

en devolvernos esta pelota a la política diciendo son ustedes los que tienen que fijar esos objetivos de lucha contra el fraude fiscal es mi diputado general es

y nosotros trabajamos para la política pero no sustituimos a la política y esto es lo que no quiere ver la señora pinedo y esto es lo que no quiere ver la señora gorospe

por qué no lo quieren ver por qué no quieren dar ese paso de cuantificación de los objetivos de lucha contra el fraude fiscal para el dos mil quince fíjese más cosas que dijeron los miembros de la comisión de lucha contra el fraude que no cito además sus nombres porque

controversia que no tienen ellos nada que ver dijeron la colaboración

claro que hay colaboración claro que hay experiencia claro que hay conocimiento claro que hay datos

por qué cada dos por tres el diputado general de cada territorio o la diputada o diputado de hacienda de cada territorio

hablando del afloramiento de la lucha contra el fraude y sin embargo

ni resultados porque no se quiere asumir esa responsabilidad

la iniciativa del partido socialista hoy aquí es llevar a la práctica desarrollar esa resolución seis una resolución seis que en el papel está muerta solo tiene vida si se pone en marcha si se pone en práctica si se le da continuidad y para darle continuidad claro que hay que fijar objetivos oiga que esto lo aprobamos el veintiséis de septiembre del dos mil trece que ha pasado el dos mil trece el dos mil catorce

a objetivos evaluables políticamente en esta cámara si no ponemos los instrumentos y usted se quiere esconder detrás de la comisión de la lucha contra el fraude y usted se quiere esconder no sé en qué porque ha hablado de todos menos de la iniciativa

espero que haya ambición política en este parlamento espero que de verdad se quiera mandar mensajes claros

el fraude fiscal hacia la ciudadanía
amaitzen joan prieto jauna ahora termino y eso es tan sencillo como un objetivo

y sobre el que habrá que dar la cara de lo que se pretende conseguir en recaudación de esa lucha contra el fraude fiscal pero si esto hay una mayoría que no lo quiere de momento no se podrá pero se terminará imponiendo no tengan

el plan del estado el que se publica en el boletín al menos no determina objetivos cuantitativos

llevan muchos años presentando resultados en las juntas generales de los territorios históricos dice usted que pretendo esconderme

zure baimenagaz prieto jauna jarraituko dot dice usted que pretendo

no en absoluto pretendemos escondernos detrás de esa comisión

cuenta con la total confianza de nuestro grupo parlamentario y lo que proponemos es que les dejemos trabajar y que les otorguemos esa confianza

sí gracias presidenta brevemente para aclarar un par de cuestiones al señor damborenea vamos a ver upyd lo que defiende es una fiscalidad única para el conjunto de europa

hasta que podamos alcanzar una fiscalidad lo más homogénea posible para el conjunto de europa evidentemente pueden pasar todavía muchos años y ese objetivo es difícil de que lo logremos en breve lo que nosotros décimos es que mientras tanto al menos aquí dentro de euskadi lo que hay que hacer es dar pasos qué pasos proponemos nosotros que las competencias

pasen de las juntas generales a este parlamento para que al menos tengamos una fiscalidad única para el conjunto de euskadi pero digamos que es una etapa

una política fiscal lo más homogénea posible para de europa ya digo que en ello estamos y upyd apoya esta propuesta de upyd en euskadi no es una visión nacionalista

de sentido común por lo tanto el primer paso indispensable que todavía no se ha dado en absoluto que las competencias fiscales pasen de las juntas generales de los territorios históricos parlamento habrá que ir dando pasos y desde luego hará falta también una reforma constitucional que vaya en esa línea pero en todo caso el conjunto de upyd está de acuerdo con esta propuesta y lo entiende como usted porque hemos hablado de esto en innumerables ocasiones y en relación a la propuesta del grupo socialista la verdad es que yo tampoco entiendo tantas dificultades de los demás grupos para votar a favor de esta iniciativa que nosotros

ninguna enmienda de totalidad nos parece correcto exigir que la comisión

que pueda ser evaluada me parece razonable más allá de que pueda ser o no complicado o que pueda tener sus dificultades me parece que el objetivo es razonable y por lo tanto vamos a votar a favor

iniciativa lo cierto es que señor txarli prieto el partido nacionalista vasco no lo ve

que se aprobaron en este pleno en fin cada uno elige sus compañeros

se demuestra otra vez que ese pacto fiscal de país que ustedes alcanzaron en fin no está siendo tan beneficioso para el conjunto de la ciudadanía y que en todo caso es muy

paso a paso para tener exactamente la misma fiscalidad en europa en españa

para pasarla de los territorios históricos al parlamento vasco es el mismo paso que para quitar el concierto económico

es decir no es la constitución la que dice que el concierto económico es de la comunidad autónoma ni un derecho histórico de la comunidad autónoma dice lo que dice o sea es el mismo paso entonces

tiene que tener no se qué capacidad fiscal es el mismo paso

por qué no se revisan las normas forales de regularización fiscal

a unas les llamamos amnistía fiscal y a otras les llamamos regularización por eso al final sirve para recaudar más vale

a la señora gorospe el plan del estado sí tiene cuantificado sus objetivos sí los tiene

o según entienden en bildu hacen trampa porque ponen menos de lo que tendrían bueno vale pero tenerlos los tiene ahora

él ya ha entendido más o menos en qué consiste la diferencia entre una y otra en el dos mil quince y entonces usted dice que en el dos mil quince tiene que haber esa previsión y se limita al dos mil quince y en la del pnv dice que en el plan conjunto que anualmente debe aprobarse por lo tanto sirve para más que el quince sirve para los demás

una pequeña discrepancia conmigo mismo porque me parecían bien las dos pero claro casi prefiero aprobar la del pnv y no tenemos que estar cada año planteando que la comisión ponga objetivos en el plan y nos ahorramos este debate el año que viene entonces ya puestos en esa tesitura quizás haya que hacer eso y respecto a lo de los técnicos vamos a ver una cosa es que el plan tenga previsiones de ingresos y otra lo que usted ha planteado hoy aquí en la tribuna que es la previsión

vamos a ver como previsión de ingreso presupuestario la recaudación prevista en los planes en cada territorio está incluida en la previsión de recaudación pero tampoco tiene usted una previsión

de sociedades de patrimonio de tasas tienen conjunto la provisión de ingresos fiscales que tienen las diputaciones se cuantifica en una cantidad global que es la suma de todas ellas sí

y evidentemente la recaudación por fraude fiscal está incluida entre los impuestos concertados que luego recibe el gobierno vasco por eso los técnicos le dijeron a usted en la comisión

por supuesto que no son quiénes ellos sí son quiénes para decir a los políticos como previsión de ingreso en el plan de lucha contra el fraude estimamos que esta puede ser la cantidad pero de ahí a considerar como ingreso presupuestario a efectos de los presupuestos o de la previsión de ingresos de los presupuestos y me da igual de qué institución hay un trecho que evidentemente

pues casi tampoco porque es que sino tendríamos que hacer una diferenciación claro impuesto por impuesto y recaudación por recaudación fiscal cualquiera que fuera y al final hacemos la suma y al final pues tenemos presupuesto de ingresos pues este año diez mil seiscientos millónes

de lo que se recauda en la lucha contra el fraude fiscal o

no no creo que nadie pensemos aquí que durante todos estos años

evidentemente estaba y de hecho sigue sin llegar ese aguinaldo pese a las mayores recaudaciones de los ingresos fiscales por causa

egun on berriz ere señor prieto usted ha iniciado su primera intervención

de las de sentar para los futuros de la política fiscal de país y el famoso veintiséis de septiembre del dos mil trece y es que no es la primera vez

como si fuera el año cero vitoria año cero nueva era y es que parece que todo gira

le recuerdo propuestas de resolución presentadas por su grupo

le recuerdo propuestas de resolución presentadas por su grupo junto al partido nacionalista vasco y le recuerdo que en aquel debate en una de las resoluciones le tuve que decir señor prieto

usted verá señor prieto pero se lo advertí y aquí estamos que usted dice que en la propuesta de resolución decía a y la señora gorospe dice que decía b pero ustedes la presentaron conjuntamente ustedes sabían lo que estaban presentando

o es que no sabíamos muy bien lo que presentábamos es su problema con el partido nacionalista vasco no me traslade a mí el problema y no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho señor prieto porque yo no he dicho las cosas que usted ha dicho que

que yo estoy diciendo que si no quiero que se pongan objetivos que si no sé que yo he dicho he dicho y lo he dicho en euskera y en castellano nadie diga que no ha entendido o ha dejado de entender he dicho que tanto los técnicos como la diputada de hacienda de gipuzkoa que otra vez fue la única diputada de hacienda que vino a este parlamento a explicar

la única sí sí he dicho que dijeron que estaban trabajando en homogenizar datos y objetivos y demás

y usted sabe que cuando dicen lo que aflora cada año cada uno da unos datos y no todos miden de la misma manera y es que usted insiste en que

su tótem es decir cuánto se recauda en la lucha contra el fraude fiscal

y solo se ha centrado en la localización y cobro del fraude eso es lo único que le preocupa del fraude yen la comisión se lo dije usted está siempre en

y no en vamos a intentar que no se defraude vamos a intentar tener un sistema que corte las vías de fraude y de elusión y lo otro habrá que hacerlo evidentemente porque siempre habrá alguien que defraude pero vamos a hacer prevención

jolines pónganse de acuerdo fue su resolución aclárense y luego nos cuenta

porque mi grupo no estuvo en esa firma estuvieron partido socialista y partido nacionalista vasco aclárense ustedes

y los resultados de la lucha contra el fraude insiste hay que cuantificar y son la recaudación mire la reducción en las devoluciones por ejemplo

es recaudación no señor prieto no es recaudación es una reducción en las deducciones una reducción en las devoluciones de las haciendas

por lucha contra el fraude no señor prieto es simplemente una corrección de bases negativas que tendrá efectos en los siguientes ejercicios corrigiendo esas deducciones que a algunos les gusta tanto poner que algunas veces no sabemos muy bien para qué sirven y sirven para esto señor prieto

para que todas las facturas vayan con iva esto es un mayor es un incremento de la recaudación

es una lucha contra el fraude pero no se traduce en incremento de recaudación se traduce en que el sistema sea más justo y podamos hacer todos una lucha contra el fraude desde el origen es decir prevención nosotros sinceramente lo hemos dicho en la lucha contra el fraude nosotros estamos

porque les gusta a ustedes al señor maneiro a todo el mundo les encanta esa resolución

vamos a decir otra vez que esta resolución nos gustaba y estaba muy bien hecha

y seguimos dándole vueltas a lo mismo vamos a hacer el trabajo dediquémonos a hacer el trabajo y cuando le he hablado de la agencia tributaria usted me lo había puesto de ejemplo

porque señor prieto cuando uno pone un ejemplo tiene que saber si ese ejemplo es para seguir eskerrik asko pinedo andrea gai zerrendako seigarren puntua

muchas gracias presidenta buenos días a todos lehendakari consejero

efectivamente vamos a votar a favor del acuerdo alcanzado estamos

entendiendo que hay que avanzar siempre que hay oposiciones suele haber

pues también que suele ser las que suelen afectar generalmente a los procesos selectivos

y en algunos departamentos pues especialmente como es el departamento de sanidad pero bueno pero en cualquier caso yo creo que lo bueno es seguir avanzando seguir avanzando en

en evitar o en tratar de hacerlo en la medida de lo posible siempre será imposible que haya recursos o que haya problemas de información

en mejorar los procesos de selección y las condiciones en las que estos se dan está bien claro que en ese sentido

en relación con la marcha de medidas que garantice más transparencia y control público tiene que ser así y eso es una labor que el gobierno tiene que realizar facilitar la participación de los sindicatos en todos los procesos de modo que se garantice una mayor

yo creo que eso de alguna manera ya se hace o ya se tiene que hacer o está garantizado

determinados sindicatos un poco más de implicación constructiva o proactiva en facilitar los procesos de selección eso es

no vamos a ser nosotros quienes lo pongamos o afeemos el acuerdo desde luego que facilitar esa participación de los sindicatos pero también con una actitud más proactiva muchas veces de algunos de los sindicatos que en algún caso llegar a entorpecer determinados procesos o procedimientos efectivamente

la duración de las mismas efectivamente a veces que procedimientos o opes se alargan mucho y hay que ajustarlo a términos previos y claros y rigurosos que se fijen unos criterios exhaustivos de baremación de los méritos en las bases de las convocatorias de los procesos selectivos eso debe ser así

yo creo que ya lo dice pero en cualquier caso si hay que profundizar si hay que avanzar en evitar arbitrariedades o esas interpretaciones tan discutibles muchas veces en tribunales calificadores o en interpretaciones de determinados

son los gobiernos los que tienen que avanzar mejorando esas cuestiones esos criterios exhaustivos de baremación

aras de la transparencia ser lo más claro posible publicar las actas de los tribunales para el conocimiento

de protección de datos y en la normativa vigente en relación con la publicitación de estas cuestiones y garantizar a las personas

efectivamente hay veces que se hace dificultoso para los opositores acceder a sus expedientes y

es bueno dar pasos en ese sentido por lo que efectivamente como ha dicho antes la proponente el acuerdo alcanzado contará con la aprobación de nuestro grupo muchas gracias

barrio jauna mistoa upyd únicamente para decir que estoy de acuerdo con la transaccional que se ha firmado y que votaré a favor de ella

porque evidentemente hay coincidencia general todos estamos de acuerdo en que en nuestro diagnóstico previo de que hay cosas en las opes que se pueden mejorar

sobre todo porque los ciudadanos que aspiran a una plaza tienen derecho a ello y porque la administración también debe trabajar en su propia credibilidad y debemos evitar que haya asuntos en los tribunales en las ope

todos los esfuerzos que se hagan para mejorar la información a los aspirantes para mejorar la transparencia y para dar a conocer a los ciudadanos

son bienvenidos por tanto nada más que felicitarnos por la coincidencia en el diagnóstico y también la coincidencia en los pasos que hay que dar para ir mejorando los procedimientos

blanca era el siguiente todavía